frente a esto es lo que hay tenemos la certeza de que cada vez que no se resigna y que está dispuesta a cambiar a cambiar porque nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas e hijos depende de ese cambio porque sabemos que hay aspectos en los que ya vamos demasiado tarde por eso proponemos una transición una transición feminista ecológica avanzada en lo social en un sistema público reforzado una transición en la que pongamos las vidas de las personas en el centro los cuidados en el centro herritarrak

errespetatuz proponemos una transición para un cambio de rumbo porque si seguimos haciendo lo mismo nunca el resultado podrá ser diferente nunca podremos responder a la gente como se merece hablemos por tanto de lo que nos preocupa somos madres padres cuidadoras tenemos amigas en los institutos ikastolas escuelas a nuestro hijo le han hecho un pcr ha dado negativo

tenemos hijos con trabajos precarios con no precarios en paro miles de personas

del comienzo del curso escolar maestras profesores maestros padres madres chavales chavalas chicos y chicas que afrontan con temor un curso lleno de dificultades

eskuartean dugun kurtso hasiera hau será como decía responsabilidad directa de la administración

pero para el resto de cuestiones es urgente tomar decisiones sobre el número máximo de alumnos por aula no podemos desaconsejar reuniones de más de diez personas en casa y juntar

aula hay que bajar los ratios a quince lo que requerirá contratar contratar más personal

vamos a ponernos a adaptar los contenidos curriculares de verdad vamos a cuidar también la salud de las y los profesionales y el alumnado de manera integral

desde el acuerdo desde la cooperación dando la palabra a profesores profesoras trabajadoras sindicatos ayuntamientos madres padres y al alumnado demostremos que

también para ir construyendo las bases de la educación del futuro

en gasto sanitario público no solo está por debajo de la media europea sino que ha

que tuvimos en dos mil nueve y eso que es fruto de las prioridades que han establecido los últimos gobiernos aquí tiene un coste sufre la salud de la gente egoera hori

lehentasunak ondo ezarriz eta horietako bat da osasun publikoa la salud pública no solamente es el conjunto de instrumentos que deben permitirnos

la salud comunitaria un aspecto que las últimas administraciones han relegado

la salud pública es la que garantiza que comemos alimentos sanos

estudiar cuáles son los problemas de salud que más inciden la que hace seguimiento

cuál es la mejor estrategia como sociedad para hacer frente a los problemas la misma salud pública

ha estado absolutamente desbordada por una carencia de medios estructurales en atención primaria en los centros de salud en dos mil nueve estábamos gastando algo más de quinientos cuarenta millónes de euros y en dos mil dieciocho no llegamos a quinientos treinta millónes

números absolutos números que nos permiten explicarnos mejor

es necesario por ello el refuerzo de la plantilla contratando ahora mismo ahora mismo al menos trescientos profesionales

con un descenso continuo en los últimos ocho años

behar den koordinazio guztiaz eskubideen aitorpena eta zerbitzuen kudeaketa integrala el actual caos de los servicios sociales con la ciudadanía desorientada

con notables diferencias según el territorio en el que vivimos debe terminar y debemos elevar los servicios sociales a un servicio público esencial

en definitiva contar con servicios públicos sólidos bien equipados que trabajan cada día en favor de la ciudadanía que innovan debe ser una de las señas de identidad de este pueblo

que se sientan orgullosos del servicio público en el que trabajan con trabajadores y trabajadoras que se sientan bien pagados en el servicio público en el que trabajan porque

o la televisión pública no son y no pueden ser patrimonio de ningún gobierno son patrimonio de toda la sociedad horiek

menos dañada ha resultado su economía y dentro de esa eficiencia

se incluye el sostenimiento por el tiempo necesario de las medidas restrictivas eludiendo la errónea tentación de levantar de forma prematura

las medidas de protección colectiva tentación que en algunos casos han caído algunos países y que nos lleva a un deterioro

el mejor ejemplo lo vemos en el reino unido o en españa pero lamentablemente también

tanto desde el punto de vista sanitario como económico ya estábamos a la cola de europa en datos de paro en general no digamos ya en los referidos al paro juvenil en que doblábamos la media europea y los de brecha salarial entre hombres y mujeres que se acerca al veinticinco por ciento datu kuantitatiboak

acuerdo nacional por el empleo de calidad euskal herria bildu se compromete a impulsar un salario mínimo de mil doscientos euros una semana laboral de treinta y cinco horas

que quieran contratar con la administración garanticen condiciones dignas de trabajo a sus trabajadoras y trabajadores tal como pide europa un marco de relaciones soberano y adaptado a la realidad y los retos de nuestro tejido productivo

para redefinir lanbide que debe ser de verdad el sistema vasco de empleo con participación de todos los agentes una nueva ley de economía social

programas masivos de ayuda a la contratación de jóvenes en sectores emergentes y estratégicos

años paradas así como para las comarcas de nuestro país que tienen tasas de paro más elevadas el refuerzo de planes e inspección de la salud y de la seguridad laborales porque morirse en el trabajo no puede ser una opción porque tenemos que acabar

berritzeko neurriak artikulatzeko ahora más que nunca es necesario el liderazgo público un liderazgo que se exprese a través

el diseño de objetivos estratégicos y la dotación de fondos suficientes para la reactivación primero y la renovación estructural después de nuestro tejido productivo en este sentido propongo la adopción con carácter inmediato de una serie de medidas de apoyo financiero a la industria a la industria vasca medidas estructuradas

extender hasta mil quinientos veinticinco millónes la partida habilitada para avalar a las empresas

cierre por falta de liquidez en segundo lugar protección y rescate proponemos la creación de un protocolo integral de atención a las empresas en crisis incluyendo la posibilidad de rescate mediante una entrada pública en el capital creando para ello un fondo

y en tercer lugar una inversión estratégica proponemos la activación de un fondo de trescientos veinticinco millónes para realizar operaciones

de la legislatura se sumarían al menos seiscientos cincuenta millónes más para totalizar novecientos setenta y cinco millónes de inversión helburuak dira

edo sendagaiak eta horretarako ere bideratu beharko direla ahaleginak es preciso una acción decidida e insistiré una vez más es imprescindible para ello invertir en investigación no solo estamos lejos de europa sino que además durante las dos últimas legislaturas

han ido retrocediendo mientras se destinaban recursos a la propaganda en inversión en investigación y desarrollo estamos

que de alemania y en esta situación creemos que tenemos que dar pasos para revertir lo que tenemos entre manos porque una vez más

son quienes más invierten en investigación en cuatro años debemos avanzar hacia el club de países avanzados

para invertir el tres por ciento del pib en investigación y desarrollo ostalaritza

que nuestra producción de renovables siga a la cola de europa que no avancemos en materia de soberanía alimentaria que continuemos dilapidando millónes de euros

o que continúe el descontrol en los vertederos como hemos visto en zaldibar joaquin beltranen gorpua aurkitzeko atsedenik gabe

los retos que afrontamos son sin duda complicados y sin duda también

la solidaridad será el gran valor que nos acompañe en esta empresa o fracasaremos y en este sentido quiero detenerme en un aspecto crucial para nuestro futuro la solidaridad intergeneracional porque en los próximos diez años

van a terminar su vida laboral la mitad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país casi medio millón de personas se van a retirar de aquí a dos mil treinta

pero al mismo tiempo cada vez hay menos nacimientos en nuestro país un reto colosal un doble reto económico y demográfico que debemos empezar a planificar ya con la creación de una oficina específica en lehendakaritza que lidere una estrategia nacional publica para garantizar

de nuevas formas de hacer política porque la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto determinados aspectos que euskal herria bildu

la importancia de contar con unos servicios públicos sólidos la necesidad de combatir las lamentables condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores que son los que han demostrado los realmente esenciales para mantener el pulso de este país la imperiosa obligación de desarrollar políticas feministas la necesidad de cooperar en todo el mundo

el centro del debate político pero aquí en euskal herria además el virus ha dejado de manifiesto cuál es nuestro nivel de autogobierno tenemos un autogobierno

es falso que haya un debate social y otro nacional el debate es hablamos de derechos hablamos de derechos de la ciudadanía no se puede abordar el debate nacional sin plantear cómo queremos construir este país pero tampoco se puede hablar de derechos sociales obviando que no tenemos capacidad de decidir que siempre

gai guztietan en definitiva lo que les propongo es una apuesta clara por la modernidad por el futuro por abrazar ya el siglo veintiuno con todos los instrumentos necesarios una nueva forma de hacer política

el mirar por encima del hombro las sospechas de corrupción el amiguismo una apuesta por una sociedad de mujeres

euskaldun y multilingüe que asegure condiciones de vida dignas a todos y a todas sobre todo a quienes más lo necesitan que les permita desarrollar sus proyectos de vida

y con esperanza una sociedad que aspire a la felicidad una sociedad en libertad este pueblo ha mostrado a lo largo de la historia

han sido y siguen siendo poderosos los que tratan de empujarnos hacia la resignación y al encogerse de hombros los que nos repiten una y otra vez

no es cierto y les doy mi palabra de que no nos vamos a resignar si esto es lo que hay la respuesta es cambia vamos a cambiarlo

comparezco presentando un programa para dar respuesta a los retos de nuestro país euskadi ha consolidado un modelo de desarrollo humano sostenible

el crecimiento sostenible es el eje de desarrollo económico contamos con un modelo que funciona lo digo sin triunfalismos ni autocomplacencias estériles

vamos a seguir trabajando con el conjunto de la sociedad vasca una sociedad que se distingue porque se preocupa y ocupa especialmente por la solidaridad

más aún en un momento de crisis tan aguda y profunda como la actual las instituciones nos encontramos nuevamente ante el reto de proteger a las personas a todas las personas a través de los servicios públicos y las políticas sociales todas las instituciones tenemos que hacer un especial esfuerzo por reforzar los cauces de coordinación y colaboración

máxima coordinación institucional la dura crisis que se anuncia tendrá su más dramático exponente en la vertiente social

en situación vulnerable por ello hay que situar en el centro del debate el alcance y extensión de nuestro sistema de protección social clave para frenar la desigualdad

sin una mínima base compartida sin el esfuerzo común de agentes públicos y privados no será posible acometer la ingente tarea que tenemos por delante

vamos a seguir innovando en ámbitos como los nuevos modelos de cuidado y salud de las personas mayores

que toda la ciudadanía tenga acceso a los recursos necesarios para una vida digna esta legislatura vamos a aprobar la nueva ley de renta de garantía de ingresos

la incertidumbre la exclusión y en su versión más extrema la pobreza en su dimensión sanitaria el virus afecta

pero en su dimensión social el efecto es tan desigual como la propia sociedad hoy euskadi necesita abordar de manera urgente reformas

generar empleo y retomar la senda que nos garantice el futuro errealismo eta erantzukizun printzipioak gure gain hartuz aurre egingo diogu etapa berri honi

eta hezkuntza eta kultura eragileei ere zuzentzen natzaie mano tendida a la colaboración el mejor proyecto posible para euskadi es el que

y pluralidad si esta cámara así lo ratifica

conscientes de que es tiempo de dialogar negociar y acordar vivimos tiempos que requieren la máxima responsabilidad del lehendakari y su equipo de esta cámara y de sus representantes políticos también

tiempos que nos exigen diagnósticos ajustados a las nuevas realidades y un renovado impulso que se traduzca en programas presupuestos equipos y personas tienen mi compromiso espero contar con el de ustedes y el de la sociedad vasca en su conjunto

hoy nuestro primer y sincero recuerdo está con todas las personas fallecidas a lo largo de la pandemia del coronavirus

en muchos casos no han podido despedir como habrían deseado solo quienes lo han padecido saben lo desgarrador de un duelo en circunstancias tan extremas

quienes nos encontramos en esta cámara hemos tenido experiencias y vivencias personales más o menos cercanas de esta tragedia las hemos sentido como propias

el próximo veintiuno de septiembre compartiremos aquí en vitoria gasteiz un acto de recuerdo y homenaje institucional

comparto el reconocimiento a quienes están ayudando desde el primer día y en primera línea a responder a la crisis de la covid unos servicios esenciales profesionales y bien organizados representan nuestro autogobierno

expreso mi agradecimiento al conjunto de la sociedad que ha sabido asumir y sobrellevar las dificultades del confinamiento una sociedad consciente y solidaria que ha afrontado las dificultades y sigue contribuyendo con tesón a contener el virus

el civismo la responsabilidad social la disciplina pueden ayudarnos lo van a hacer a superar estos momentos tan complejos ello supone asumir cada uno cada persona nuestra propia responsabilidad sin buscar un chivo expiatorio contra el que descargar nuestra impotencia y nuestros miedos

como realismo constructivo el realismo constructivo supone reconocer que las cosas no están bien y que exigirá mucho esfuerzo salir adelante

impacto emocional que conlleva vivir estos duros momentos se impone la voluntad de creer en nuestra propia capacidad para sobreponernos y recuperar el pulso social

el arranque y desarrollo del curso académico dos mil veinte dos mil veintiuno la educación es un pilar básico para el progreso y la equidad social una prioridad la pandemia golpea a todos los sectores y actividades sociales también

lo hemos padecido durante el último cuatrimestre del curso pasado un gran esfuerzo de toda la comunidad educativa permitió a afrontar el reto de la no presencialidad obligada

utilizando los recursos disponibles y creando interacciones didácticas inéditas de cara a la preparación de este curso hemos trabajado con tres criterios

y adaptación previsión a finales de junio el gobierno vasco definió y compartió un protocolo de actuación que contemplaba tres escenarios para el inicio del curso coordinación este documento

fue remitido a todos los centros educativos se mantuvieron veintitrés reuniones de trabajo con la comunidad educativa sobre esta base cada centro atendiendo a sus propias características ha ido elaborando su plan de contingencia para iniciar el curso este es el punto de partida adaptación

por este motivo la pasada semana hemos procedido a adaptar el protocolo de junio a la realidad de finales de agosto en base a este criterio de adaptación el inicio de curso se desarrollará de forma escalonada

una semana más tarde el quince de septiembre tercero y cuarto de eso y bachillerato en formación profesional el comienzo se prevé

salud y educación son y deben ser compatibles la apuesta del gobierno vasco en colaboración con la comunidad educativa es el denominado escenario uno esto es la educación presencial en todos los niveles educativos esta es la mejor garantía para una educación de calidad y en condiciones de igualdad

compensatoria contribuye a corregir la desigualdad del alumnado más vulnerable o con dificultades académicas sociales digitales o familiares el protocolo de actuación para este escenario uno incluye todas las medidas orientadas a garantizar las condiciones preventivas

de integración aforo máximo de alumnado por aula en cada etapa y uso de la mascarilla oinarri hau hartuta ikasturtea hasteko

hori da erronka gainditzeko bide bakarra nos corresponde afrontar con éxito el reto de consolidar un servicio educativo universal de calidad avanzar en la excelencia a partir de su modernización clave para la cohesión social defiendo con claridad el sistema y el modelo educativo vasco es una prioridad del país es una prioridad del gobierno vasco esta legislatura aprobaremos una ley vasca de educación

hamabostgarrena zintaren amaiera hamaseizintaren hasiera es una prioridad del país es una prioridad del gobierno vasco esta legislatura aprobaremos una ley vasca de educación tomará en consideración el acuerdo alcanzado la pasada legislatura

se orientará a modernizar el sistema educativo vasco avanzar en el plurilingüismo garantizar la igualdad de oportunidades revisar la financiación del sistema educativo

como he dicho con anterioridad vivimos un momento excepcional es cierto que la lucha contra la covid lo ocupa prácticamente todo ahora bien el programa de gobierno ni debe ser monográfico vamos a seguir impulsando todos los objetivos de país la pandemia no ha anulado esos objetivos que son ahora incluso más necesarios que antes objetivos estratégicos en los distintos ámbitos económicos sanitarios educativos industriales

un nuevo escenario para una nueva etapa reitero mi agradecimiento al partido nacionalista vasco y al partido socialista por el trabajo realizado para consensuar este acuerdo desde una visión compartida del futuro de euskadi emprendemos juntos un camino al que debemos sumar nuevas voluntades

tanto de la convicción como de la necesidad ahora cuando contamos con una mayoría más asentada el espíritu va a ser el mismo la convicción

presentamos un acuerdo para el futuro de euskadi abierto a todas las aportaciones y contribuciones también a las críticas constructivas como desearía que fueran

el momento que vivimos así lo reclama la dimensión de los retos y objetivos que planteamos demanda extender la cultura del acuerdo y la colaboración

lo vivido durante los últimos meses va a marcar el futuro de los próximos años esto nos permite analizar las claves del momento actual uno la importancia de las instituciones y las políticas públicas en un tiempo en el que

se ha hecho más patente que nunca la importancia de las políticas públicas y la acción de las instituciones han cobrado un nuevo valor el conocimiento y la ciencia

la educación el apoyo a las personas más vulnerables o la seguridad dos la experiencia de la vulnerabilidad social y económica

la covid ha traído la crisis social y económica más grave de las últimas décadas ha provocado la destrucción de parte de nuestra economía y de miles de empleos

de muchas familias y personas algunas de las dificultades ya las hemos padecido y superado en situaciones anteriores pero la profundidad de esta crisis nos obliga a ir más rápido y mejor a la hora de proteger lo común y avanzar en la igualdad

reequilibrio entre lo global y lo local vamos a seguir viviendo en un mundo interconectado y global pero hemos apreciado la importancia de lo cercano

y un tejido social y económico local fuerte hemos comprobado el valor de contar con un hábitat más saludable con ciudades quince minutos de tamaño medio con viviendas que garanticen las condiciones de vida familiar ha cobrado más valor la protección de la biodiversidad con espacios verdes y una movilidad sostenible

cuatro europa es nuestro proyecto el ambiente de tensión internacional era previo a la pandemia

hay una pugna geoeconómica y política global europa no se puede quedar al margen hay quien considera que europa debería haber ido más lejos en todo caso

la necesidad de un impulso económico y social por eso promueve ejes fundamentales para nuestro futuro como la sostenibilidad y la transición energética

la tecnología y la digitalización cinco reactivar el tejido económico y empresarial es una necesidad porque el empleo

no solo por la caída de la actividad o de actividad que obliga al reajuste permanente de todas las previsiones sino por su impacto en el empleo la destrucción de negocios empresas o actividades profesionales es muy fuerte estamos sumidos en una crisis económica sistémica

la hostelería la cultura o el ocio con gran afección en sectores clave para nuestro país como la automoción aeronáutica o bienes de equipo

la creación de empleo vuelve a ser nuestro objetivo fundamental por ello tenemos que sostener a nuestras empresas y hacer una apuesta por el futuro de la industria y los servicios avanzados

dos lo importante las personas tres lo responsable el planeta nuestro compromiso con una transición energética y climática justa vamos a impulsar un gran acuerdo social por el clima en euskadi green deal en línea con el acuerdo cop veintiuno de parís

destaco sus cinco prioridades energías renovables cambio climático biodiversidad economía circular movilidad y transporte sostenible

incluyendo la apuesta por las renovables invertiremos tanto en la conservación del medio natural y la biodiversidad como en el impulso a la economía circular esta legislatura aprobaremos la ley de patrimonio natural y también la ley de cambio climático seremos un país

contribuiremos a evitar el incremento de la temperatura media global

lo pendiente el autogobierno y la convivencia nuestro compromiso es lograr más y mejor autogobierno para avanzar en el desarrollo humano sostenible

de conformidad con el cronograma de traspasos pendientes

esta legislatura nos planteamos alcanzar en este parlamento un acuerdo básico por el futuro político de euskadi el estatuto supuso el reconocimiento

una identidad singular diferenciada constituida por la titularidad de los derechos históricos estos derechos servían así y no fue otra la intención de la adicional primera de la constitución de engranaje entre el sustrato foral y el constitucionalismo del estado moderno

seguridad jurídica respeto a los procedimientos y voluntad política para permitir la consulta directa a la ciudadanía en torno a cuestiones de especial transcendencia euskal autogobernua eguneratzeak

lan eremua izaten jarraituko du elkarrizketa sozialeko mahaian hemos institucionalizado esta mesa de diálogo social

calidad del empleo formación profesional dual control del fraude laboral incorporación de la mujer a la formación en ciencia tecnología e innovación también a la industria o el compromiso contra la brecha salarial

apostando por esta mesa de diálogo social como espacio de encuentro y colaboración entre todos los agentes sociales y económicos de nuestro país la puerta está abierta desarrollo humano como primer eje de nuestro modelo segundo eje crecimiento sostenible

debemos recuperar la senda de crecimiento que logramos antes de la pandemia del coronavirus es nuestro propósito común contamos con una experiencia positiva acumulada

aprobaremos entre otras la ley de desarrollo rural o la ley del sistema público o del sistema vasco de empleo nuestra estrategia de crecimiento sostenible se sustenta en dos pilares creación de empleo y reactivación económica estos dos objetivos están alineados con la estrategia de recuperación y resiliencia de la unión europea

estos objetivos son compartidos y van a ser trabajados de forma conjunta por las instituciones vascas diputaciones forales ayuntamientos y gobierno vasco compartimos la prioridad absoluta de la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo

orientados a generar más crecimiento y el máximo empleo posible el año dos mil trece primer año completo como lehendakari euskadi se encontraba en recesión y el paro crecía mes a mes hoy volvemos a estar en una situación complicada

el año dos mil diecinueve habíamos logrado el objetivo nuclear de reducir el paro por debajo del diez por ciento esta era nuestra prioridad y ahora por efecto de la pandemia

nos toca nuevamente llevar a cabo una tarea de reconstrucción nuestro primer compromiso es una gestión rigurosa responsable transparente y eficaz

somos un país solvente y vamos a mantener el rigor en la gestión de las cuentas públicas nuestra primera tarea en los próximos cien días

programa de gobierno que incluirá los quince objetivos de país directrices económico presupuestarias en las que mantendremos nuestro compromiso de recortes cero en los servicios públicos esenciales estrategia de empleo y reactivación económica compartida con las instituciones vascas y abierta a la colaboración público privada proyectos para los fondos next generation de la unión europea con la ambición de poder movilizar

plan de digitalización de la educación plan de sostenimiento financiero de las empresas vascas con los fondos de arraigo y desarrollo empresarial

programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas profesionales autónomos comercio hostelería cultura y turismo avance del calendario legislativo y presupuesto dos mil veintiuno la actitud del gobierno en la respuesta a la situación y los retos de futuro se va a asentar en el dialogo y

compartir una estrategia establecer unos objetivos realistas y facilitar la colaboración entre las instituciones públicas y con la iniciativa privada esta es la actitud que vamos a primar para convertir los retos en oportunidades

nuestros derechos históricos la actualización de los derechos históricos debe abarcar un mecanismo de bilateralidad

bajo un esquema de concertación hemos avanzado en la ponencia de autogobierno de este parlamento disponemos de una base sólida que nos permite ser positivos para poder contar con un nuevo estatus político de futuro para euskadi tenemos que culminar el trabajo iniciado la anterior legislatura

la pluralidad interna es un elemento constitutivo de nuestra manera de ser el reto es construir desde la diversidad de identidades acordar y pactar

el pacto conecta con nuestra mejor tradición foral una tradición sobre la que se han construido los dos procesos estatutarios de mil novecientos treinta y seis

nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo pacto estatutario de futuro

la singularidad del autogobierno vasco asiente una relación bilateral con el estado y favorezca la presencia y proyección internacional de euskadi

el marco del acuerdo es este parlamento planteo cuatro reflexiones

primera se trata de debatir negociar y consensuar el reconocimiento de la capacidad de vascos y vascas para acordar

segunda reflexión la oportunidad de fortalecer nuestro autogobierno se asienta en un nuevo estatuto que suponga la actualización de nuestros derechos históricos la actualización del autogobierno entronca con un arraigo más profundo en los derechos históricos que ampara y respeta la constitución y que a renglón seguido

al estatuto tercera las relaciones entre euskadi y el estado se abordan desde los principios de reconocimiento mutuo lealtad

coordinación competencia y mecanismos bilaterales de salvaguarda de las singularidades de las materias propias forales cuando el estado pueda incidir en ellas

cuarta reflexión se trata de fortalecer las relaciones de euskadi en el ámbito europeo y el exterior así como favorecer la participación

convenios y acuerdos internacionales el reto es alcanzar en esta cámara un consenso sólido en torno a un proyecto político de futuro un consenso que permita materializar el deseo mayoritario de la sociedad vasca concretado en la actualización y profundización de nuestro autogobierno esta es la mejor inversión para seguir consolidando los servicios públicos la respuesta a la pandemia y el sistema vasco de bienestar

nuestra mano está tendida para extender la cultura de la colaboración he adelantado que nuestro programa de gobierno contemplará quince objetivos de país destaco hoy cinco de especial relevancia impulsar la reactivación económica para poder situar el paro por debajo del diez por ciento

reducir un treinta por ciento la emisión de gases de efecto invernadero y lograr el veinte por ciento en energías renovables

y reforzar la atención primaria estos objetivos representan nuestro compromiso con la respuesta a las principales demandas y necesidades de la sociedad

garantizo un gobierno vasco asentado en una visión realista y cercana de los problemas garantizo los valores de la integridad y la honestidad

trabajar con rigor responsabilidad y perseverancia

en pos del bien común euskadi es un ejemplo de colaboración la diversidad política nos ha obligado a buscar y trenzar acuerdos la arquitectura institucional vasca nos ha mostrado la necesidad de cooperar las graves crisis que hemos vivido los últimos cuarenta años nos han enseñado que la colaboración público privada es la mejor vía para avanzar

nos ha demostrado el valor de la convivencia social me presento ante este parlamento con el acuerdo de gobierno firmado entre dos partidos políticos distintos

y muy avanzado remarco ante este parlamento algunos de los compromisos que hemos priorizado plan de empleo juvenil que facilite una primera experiencia laboral a treinta mil jóvenes

destinar ciento cuarenta millónes de euros a planes locales y comarcales de empleo con especial incidencia en las comarcas de actuación preferente planes especiales de inspección de trabajo para regularizar y transformar los contratos laborales en indefinidos

y servicios avanzados supongan el cuarenta por ciento de nuestro producto interior bruto impulsar ciento veinte proyectos estratégicos de investigación incorporar cien nuevas personas investigadoras de excelencia a la red ikerbasque

mejorar la tasa de continuidad del profesorado en los centros públicos por encima del ochenta por ciento extender la formación profesional dual a todos los ciclos formativos

se adhieran a este sistema servicio de teleasistencia para todas las personas mayores de ochenta años

que posibilite la conciliación de la vida laboral y familiar son iniciativas y compromisos fruto del acuerdo euskadi necesita más acuerdo político para emprender los retos y reformas que debemos abordar acuerdos coordinación

también más colaboración público privada vivimos un tiempo de acuerdo pacto y consenso social el nuevo gobierno vasco pone en común

una estrategia y una visión compartida de las prioridades ante esta nueva etapa promovemos un contrato con la sociedad

económica social y del empleo compartir la recuperación emocional de la sociedad vasca un contrato social asentado en los principios de responsabilidad y corresponsabilidad la colaboración va a ser un pilar básico de nuestra acción de gobierno

desde lehendakaritza vamos a impulsar el modelo de gobernanza colaborativa

gobernanza colaborativa en el ámbito social y económico potenciando la mesa socio económica también a través de la ley de transparencia y participación ciudadana que aprobaremos esta legislatura modelo de gobernanza colaborativa para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible a través de la estrategia euskadi basque country dos mil treinta vienen meses y años duros muy duros

vamos a salir adelante vamos a garantizar el futuro de nuestro país

y un nuevo espíritu el espíritu de esta etapa es avanzar en la cultura de la corresponsabilidad ejercer una gobernanza colaborativa primar la reactivación económica y las oportunidades de empleo

y favorecer las alianzas y pactos institucionales y políticos económicos y sociales tengo la plena convicción de que trabajando juntos

y seremos capaces de sacar este país adelante euskadi de nuevo en marcha jende guztiak dio behin eta berriz